guztiok tengo el honor de comparecer ante el pleno de este parlamento para dar cuenta del informe ordinario de la institución del ararteko del año dos mil trece el pasado dos de julio comparecí ante la comisión de derechos humanos igualdad y participación ciudadana para dar a conocer este mismo informe

expuse sintéticamente las actividades realizadas por la institución di cuenta de los informes extraordinarios o monográficos así como de las recomendaciones generales y puse de manifiesto el grado de cumplimiento del deber de colaborar con el ararteko de las administraciones públicas

lo que la ley reguladora del ararteko denomina la dación general

no resulta posible en el tiempo asignado a esta intervención informarles con suficiencia sobre el nivel de protección de derechos en todas y cada una de las veintiocho áreas de trabajo más la oficina de la infancia y la adolescencia en que se organiza la actividad del ararteko me limitaré por ello a subrayar los aspectos más relevantes de la valoración que nos merecen desde el prisma de una salvaguarda última de los derechos de las personas

así como las diputaciones forales y de los ayuntamientos vascos poniendo el énfasis en los colectivos más vulnerables

el año pasado en términos globales las actuaciones relacionadas con el servicio la ciudadanía y el control de las administraciones

once mil setecientos setenta del año dos mil doce es decir un aumento de más del doce por ciento tan solo en un año

en dos mil diez hemos registrado de estas actuaciones nueve mil seiscientos diez quejas

mil diecisiete por internet trescientos cuarenta y cuatro por escrito y cincuenta y nueve de oficio

además hemos realizado otras actividades entre otras setenta reuniones con organizaciones sociales sesenta y cinco con diferentes administraciones públicas

y elaborado un informe extraordinario con respecto a las quejas ciudadanas se ha de constatar que se ha producido un incremento de un quince por ciento con respecto a dos mil doce

debido a múltiples razones pero principalmente al gran peso de las quejas relativas a las prestaciones sociales de contenido económico

se ha considerado que existía alguna actuación incorrecta en el cincuenta y seis coma dos por ciento de las quejas analizadas

ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el ochenta y seis coma veintidós por ciento de los supuestos oficina de la infancia y la adolescencia expondré seguidamente las cuestiones más significativas de la oficina de la infancia y la adolescencia que opera como todos ustedes saben en el seno del ararteko el trabajo de dicha oficina se ha traducido desde una perspectiva cuantitativa

y múltiples colaboraciones con organizaciones sociales y participaciones en foros de encuentro y debate

seguido a mucha distancia por servicios sociales de infancia en desprotección once por ciento y el resto de ámbitos todos bastantes por debajo del diez por ciento destacándose como novedosa este año

ahora bien a los referidos expedientes de queja hemos de sumar aquellos otros tramitados en el área de inclusión social que opera dentro de la oficina podemos calcular aplicando el porcentaje de familias perceptoras de rgi con hijos e hijas a su cargo

que en doscientos treinta y seis expedientes de queja presentados por familias vascas en relación con las prestaciones del sistema de garantía de ingresos hay niños y niñas afectados por la situación de precariedad económica por lo que respecta a la situación de los menores de edad de las familias que se hallan en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social debemos señalar lo siguiente

plan o instrumento contra la pobreza infantil en la que se contemple el apoyo a las familias pobres o con escasos recursos dos debemos poner en valor las actuaciones preventivas y la intervención precoz

por lo que trabajar para la equiparación de oportunidades y el desarrollo personal

tiene su corolario en su contrastada capacidad de retorno económico y de mayores

en una sociedad menos polarizada tres habría que reforzar las políticas compensatorias ya que la crisis afecta antes con más dureza durante más tiempo y con efectos más nocivos y duraderos a personas y grupos en situación de desventaja social un trabajo importante realizado por la oficina de la infancia son las actuaciones efectuadas en el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección

el elemento de preocupación común a todas ellas es el sufrimiento psicológico y emocional de los niños niñas y adolescentes

además de que se está viendo comprometido el derecho del menor a relacionarse con ambos progenitores por todo ello entendemos que sería conveniente que tanto las instancias judiciales como las administraciones potenciaran la cultura del acuerdo y la mediación a fin de ayudar a los progenitores a separarse respetando reservando y priorizando siempre el interés superior de los niños niñas

colectivos destinatarios de políticas públicas incluimos

de personas especialmente vulnerables necesitadas de políticas públicas para garantizar

otros grupos colectivos en los que ocurren estas circunstancias son objeto de apartados específicos de esta exposición

el reto de materializar el derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y a la protección de la dependencia priorizando en todas sus políticas la atención

para ello resulta clave de un lado continuar ejerciendo la potestad que ostentan de establecer niveles adicionales de protección al colectivo afectado y de otro aprovechar la excelente oportunidad que ofrece la aprobación

el retroceso evidenciado en nivel estatal y garantizar una efectiva implantación de la ley de servicios sociales del país vasco clara expresión de la competencia exclusiva en materia de asistencia social

el paradigma del envejecimiento activo basado en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los principios de independencia participación dignidad asistencia y autorrealización debe seguir impulsando el trazado de las políticas públicas con el fin último de que toda persona realice su potencial de bienestar físico social y psicoafectivo a lo largo de todo su ciclo social y psicoafectivo

deseos y capacidades siendo receptora cuando lo precise de protección seguridad

la situación de reducción presupuestaria de las administraciones no debería traducirse en la anulación de la financiación pública dirigida a la supresión de barreras que sufren las personas con discapacidad además

constituye una medida de apoyo a un colectivo especialmente dependiente de la prestación farmacéutica

exigencias de equidad la postura adoptada por la administración vasca en el sentido de no hacer distinciones a estos efectos según la situación administrativa de la persona extranjera es valorada como muy positiva por el ararteko pues afecta al derecho a la vida

ya que los datos muestran que el fenómeno migratorio se ha estructurado social económica y culturalmente en euskadi están creciendo las ideas negativas o de rechazo sobre las personas inmigrante así como la xenofobia por lo tanto se ve necesario una potenciación y un desarrollo de las políticas de acogida de inclusión social de la gestión de la diversidad y de cohesión social

resulta ineludible superar estas situaciones por cuanto que el empadronamiento en la actualidad constituye un requisito indispensable para el acceso a los sistemas de protección social sanitaria y educativo en definitiva para la garantía de los derechos sociales

no está siendo suficiente por lo que se deben reforzar los programas y las actuaciones dirigidas a este fin

debemos subrayar que la administración vasca ha mostrado ya una voluntad expresa de incorporar esta perspectiva de los derechos de diversidad afectivo sexual y de género

una buena actuación en este sentido es también el desarrollo del proyecto europeo para la educación el respeto a la diversidad afectivo sexual

lo cual nos ofrece la oportunidad de un trabajo conjunto con las instituciones educativas vascas

igualdad integridad física de las mujeres el pasado año

cuando amagoia elezkano fue asesinada en llodio como ya hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones

analizar qué puede ser mejorable en términos de protección policial y social

con el único objetivo de tratar de evitar que sigan sucediendo casos trágicos y reprobables como este desde un enfoque de género

a cuyo cargo se encuentran además la mayor parte de las personas mayores dependientes niños y niñas

se erigen así en un colectivo especialmente vulnerable a la situación de crisis agudizándose un proceso ya detectado desde hace tiempo también en nuestro entorno

de la pobreza así mismo venimos señalando ya en los últimos años que las administraciones públicas se enfrentan actualmente al desafío de poner en marcha medidas de acción positiva

en los que han estado históricamente menos presentes o menos visibles el deporte escolar en un ejemplo significativo

como sucede singularmente en el ámbito de la atención policial subsisten todavía enormes dificultades para las mujeres que pasan por el infierno de la violencia y toman la determinación

en materia de vivienda y en el acceso al trabajo con todo tenemos que reconocer también que

interinstitucional que se realiza en euskadi en este ámbito resulta indispensable para detectar estas dificultades y facilitar los medios más adecuados para apoyar a las mujeres en ese difícil proceso de salida de la violencia la nueva reestructuración institucional que se ha dado con la coordinación

resulta coherente en su formulación y deberá ser permanentemente evaluada el próximo periodo de tiempo

queremos subrayar que en el ámbito de la atención sanitaria de las personas que se hayan en las prisiones del país vasco

debe ser valorada positivamente el nuevo modelo asistencial penitenciario en materia de salud define el recurso sanitario en prisión como una parte de más de la estructura global de la asistencia sanitaria pública

es este el contexto en el que sostenemos que la asunción completa de las competencias penitenciales repetidamente solicitada

en el que no solo importe el qué sino también el cómo y sobre todo el para qué

se trata de una tendencia que venimos constatando en nuestros últimos informes refiriéndonos no solo al recorte de los medios a su servicio sino al impacto de determinadas modificaciones normativas que

la justicia repercuten negativamente en la efectividad de la tutela judicial de los derechos

en este ámbito de actividad entendemos que tenemos que reiterar una vez más la demanda de que los presos vascos que están con prisión por la comisión de un delito de actividad terrorista

con el fin de aplicar debidamente el principio de que el cumplimiento de la pena debe ir orientado

egiteko ere hoy como saben comparezco por última vez ante el parlamento para dar cuenta

coincide con el veinticinco aniversario de esta institución definida como alto comisionado del parlamento para la defensa de los derechos de las personas creo que resulta oportuno señalar en este foro que el balance de estos veinticinco años es digno de ser subrayado las ciento tres mil ciento sesenta y ocho quejas tramitadas más cerca de otras veinte mil actuaciones llevadas acabo son cifras bien elocuentes

pero quines trabajamos en él podemos decir con satisfacción y orgullo que hemos resuelto muchos problemas a miles de ciudadanos y ciudadanas toda vez que más de la mitad de las actuaciones administrativas objeto de los expedientes de queja

y aunque como se sabe nuestras recomendaciones no son de obligado cumplimiento la administración destinataria

según datos del año pasado además de ello hemos contribuido modestamente por medio de nuestras recomendaciones y de las reuniones celebradas

y de la calidad de la democracia el ararteko ha devenido

mis objetivos principales desde el comienzo de mi trabajo como ararteko han sido tres

aumentar al máximo nuestra eficacia y elevar continuamente nuestro nivel de eficiencia y de rentabilidad económica y social asimismo hemos hecho un gran esfuerzo en aras de optimizar nuestro trabajo para reforzar al máximo las relaciones de colaboración con las administraciones públicas

en concreto la aplicación y gestión de la ley estatal de coordinación entre el defensor del pueblo de españa y el ararteko y las demás defensorías autonómicas está siendo muy buena sin que se registre

los valores democráticos han triunfado cesaron pues las terribles y gravísimas vulneraciones a los derechos humanos más básicos el derecho a la vida

etcétera muchos miles de ciudadanos dejaron de estar bajo la amenaza de la muerte de la extorsión

junto con esta alegría debo expresar también una honda preocupación derivada del contexto socioeconómico

el referido contexto se caracteriza entre otros elementos por el aumento del desempleo una tasa insoportable de paro juvenil

el incremento de las desigualdades así como el riesgo de exclusión social el descenso brusco e importante del nivel de vida y de ingresos de amplias capas de la población el aumento notable de la precariedad laboral y social y de la incertidumbre ante el futuro el deterioro de las condiciones y de los derechos laborales

y el debilitamiento de la necesaria legitimación social de las instituciones públicas estos elementos dan lugar a un escenario en el que se observa desde nuestro punto de vista una quiebra del valor de la así como el llamado contrato social

todo ello dibuja un cuadro extremadamente delicado y peligroso y genera un clima muy negativo para el ejercicio de los derechos y la acción de las políticas públicas desde una óptica de defensa de derechos en este caso de los derechos sociales debo reiterar que estos derechos incluidos los

son una exigencia del ordenamiento jurídico y son también un deber ético

de todas y cada una de las personas que viven en la comunidad autónoma vasca por ello debemos reiterar la necesidad de trabajar con ahínco a favor de los valores de la solidaridad

de la inclusión y la cohesión sociales tejiendo para ello amplios consensos políticos y sociales me gustaría que nadie pudiera decir que en euskadi no se cumple o no se quiere cumplir lo dispuesto por el artículo primero de la aclaración universal de los derechos humanos para ello hay que proteger debidamente la dignidad de todas y de cada una de las personas

repito de todas y de cada una de las personas que viven en nuestro país

que constituyen desde nuestro punto de vista temas de especial importancia para la agenda pública

alcanzar los máximos niveles de transparencia en la gestión de las administraciones y en el ejercicio del derecho de acceso a la información

dando siempre respuesta a las solicitudes ciudadanas con prontitud claridad motivación suficiente y buen trato

asimismo resulta necesario reconocer y garantizar los derechos a la verdad a la justicia a la memoria y a la reparación

según denominación de la proposición no de ley aprobada por este parlamento estamos refiriéndonos como todos ustedes saben a las víctimas de la tortura y los malos tratos

y hay que seguir profundizando la garantía de la igualdad entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos incluidos los deportivos los festivos y los de ocio

de muchos grupos o colectivos humanos que aún sufren discriminación o desigualdad en su vida diaria quiero hacer una mención especial a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual así como a las personas que padecen algún trastorno enfermedad mental

hay que poner medios más eficaces para erradicar el cáncer de la violencia contra las mujeres

del sexismo del machismo del racismo de la xenofobia de la homofobia la transfobia

uno de los problemas que más ha ido creciendo en los últimos años ya lo he dicho es el relativo a la insuficiente y deficiente protección de los derechos de los consumidores y usuarios

electricidad gas telefonía fija o móvil internet hipotecas y activos financieros

voy terminando quiero alabar públicamente la labor de las mujeres y los hombres que trabajan en el ararteko excelentes profesionales

y que además de su buen hacer aportan un plus de dedicación más allá de sus obligaciones laborales por su fuerte motivación para cumplir lo mejor posible con los objetivos del ararteko que es tanto como decir para servir a los ciudadanos y ciudadanas de este país quiero

y de todo corazón la confianza y el apoyo que me han dado desde el principio y de forma continuada en el ejercicio de mis cometidos todos los grupos parlamentarios y todos los parlamentarios y parlamentarias sin esa confianza

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos el informe

refleja un aumento sensible de la actividad pero sobre todo es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad ya que las quejas que llegan a la institución son

que vivimos desde hace años los recortes sociales y de derechos llevados a cabo por los distintos gobiernos y sus gravísimas consecuencias en los ciudadanos la mayor parte de las quejas que llegan al ararteko y los expedientes abiertos son sobre las áreas que tienen que ver con esas consecuencias sin entrar a hacer un análisis exhaustivo de los datos que todos hemos podido conocer y analizar

el sesenta y uno coma cincuenta y nueve por ciento se refieren a inclusión social el ocho coma sesenta por ciento a educación el siete coma setenta por ciento a vivienda

estas cuatro áreas concentran casi el ochenta y tres por ciento de los expedientes precisamente las áreas en las que se reflejan los problemas de los ciudadanos que peor lo están pasando

en el caso de las diputaciones forales digamos que la fotografía es similar ya que la mayoría de las quejas se refieren a las áreas de personas mayores y dependencia inclusión social infancia igualdad y discapacidad temáticamente sigue siendo la inclusión social igual que el año pasado sobre la que más quejas se presentan

y particularmente los problemas generados por el mal funcionamiento de lanbide a la hora de tramitar la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda todos o casi todos somos conscientes del impacto positivo que tiene el sistema vasco de protección social para prevenir

y exclusión social ante los propósitos de determinados representantes políticos de recortar drásticamente el sistema tenemos el reto

de mantenerlo o incluso fortalecerlo en todo caso nos queda un importante asunto por mejorar que es el del funcionamiento de lanbide aunque el propio ararteko reconozca en su informe que durante el dos mil trece ha ido mejorando su funcionamiento

de la tramitación y pago de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda en todo caso

en este asunto casi el noventa por ciento de las quejas de esta área de inclusión social se refiere a la renta de garantía de ingresos prestación complementaria de vivienda

aunque supone un descenso del doce por ciento respecto al año anterior por la mejora en la gestión de citas previas y primera solicitud de la renta de garantía de ingresos aún sigue siendo una cifra excesivamente alta ya en dos mil doce el ararteko elaboró un extenso documento sobre lanbide que acababa con cuarenta y uno recomendaciones para mejorar su funcionamiento e interpretar la normativa pero muchas de ellas siguen sin aplicarse

modificaciones suspensiones y extinción de las prestaciones la falta de audiencia al interesado la demora en la reanudación de la prestación demoras en las resoluciones de las solicitudes y de los recursos entre otras el incorrecto funcionamiento de estos capítulos genera grave indefensión en el afectado

es censurable deberíamos exigir a la administración una acción rápida y contundente para evitarlo no olvidemos que suele ser una persona con graves dificultades por lo que no es de recibo que la administración le ponga más problemas

por eso es completamente comprensible y lo apoyamos que el ararteko denuncie las distintas interpretaciones de la normativa que provoca que se dificulte el acceso a las ayudas sociales y que pida criterios claros que no dejen lugar a la arbitrariedad y redunden en seguridad jurídica para los titulares de estos

nos sumamos a su reclamación que textualmente señala que resulta urgente y necesario el desarrollo reglamentario de la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social modificada en dos mil once mediante la adecuación de los reglamentos que a día de hoy

también nos sumamos a su solicitud para que se desarrolle el procedimiento sancionador ya previsto en la ley porque permitiría graduar las infracciones y las sanciones y que se ponga fin a los recortes y a las entidades sociales que trabajan en el campo de la exclusión social

deben ser prioritarias en momentos de crisis voy a destacar una segunda área del extenso informe del ararteko que es la referida a vivienda

lo están pasando las que más riesgo de exclusión padecen y compartimos su visión

exige que las administraciones refuercen los recursos destinadas a garantizar

digna y adecuada para que las personas y familias más necesitadas no queden desprotegidas y privadas de un bien de carácter absolutamente esencial y también compartimos su conclusión a la que llega después de constatar que debido a la inestabilidad económica los ciudadanos demandan prioritariamente

la conclusión es clara al señalar que esta situación debe llevar a las administraciones públicas a incrementar sustancialmente la oferta de viviendas protegidas en alquiler en upyd llevamos años defendiendo que el gobierno vasco promocione

y que destine todos sus recursos económicos en materia de vivienda en alquiler

destacar el estudio publicado en dos mil trece sobre el impacto de la crisis en la infancia la realidad vasca con cuyos datos hemos trabajado en numerosas ocasiones en este

pasa desapercibido la incidencia del paro y de la exclusión social

asunto también de extraordinaria importancia valoramos también otros pronunciamientos de la institución en relación a la violencia de género

igualdad la lucha contra la precariedad laboral la pobreza o la exclusión social y la situación grave de determinados colectivos vulnerables

cuya resolución por cierto debería ser prioritaria para todos los partidos políticos y también para el gobierno quiero agradecerle que

creo que de manera contundente de determinadas declaraciones xenófobas y racistas realizadas por determinados representantes políticos que han pretendido estigmatizar al colectivo de inmigrantes sin otro objetivo que sacar cabeza y crear polémica para tratar de lograr un puñado de votos

que todos seamos capaces de actuar con responsabilidad ante este tipo de actitudes que siembran discordia y atacan injustamente a una parte de nuestra sociedad obviamente no todo van a ser luces además de algunos

no compartimos un año más tenemos que denunciar que en su informe no aparece ni una línea sobre la reclamación de las víctimas del terrorismo para que se investiguen y se aclaren los más de trescientos crímenes cometidos por eta pendientes de resolución

tendría que haber dedicado una parte de sus esfuerzos a reclamar

que no se olvide este asunto y que se dediquen los medios necesarios para poder dar satisfacción a las víctimas en su reclamación de verdad justicia y memoria y creemos que el ararteko debería haber revindicado con más ahínco

de eta y sin ningún tipo de impunidad y tenía que haber atendido mucho más de lo que lo ha hecho las reclamaciones de las víctimas

el ararteko habla de los presos de eta a los que llama presos vascos pero no recuerda a las víctimas del terrorismo y sus reivindicaciones y en concreto

pendientes de resolución algo que a nosotros nos parece ciertamente lamentable por lo demás

la necesidad de renovar la institución del ararteko para adecuarla a los nuevos tiempos

y redimensionarse pensamos que ha llegado el momento de plantearse la modificación y revisión de la ley de creación del defensor del pueblo con cambios que corrijan la actual estructura y la redimensione algo que corresponde a este parlamento

de los que prácticamente treinta son cargos de confianza nos parece una estructura totalmente desproporcionada y sobredimensionada con unos sueldos excesivos

de manera inminente a través de este parlamento que es donde corresponde hacerlo por lo demás queremos despedir al señor iñigo deseándole suerte en su nueva vida una vez que deje el cargo en los próximos meses nada más y muchas gracias a todos por el trabajo realizado

egun on gracias señora presidenta señorías me he leído

señor lamarca y le he escuchado atentamente esta mañana la extensión densidad y detalle del trabajo que desempeña la institución que usted representa

encomiable en el grupo parlamentario popular somos muy conscientes de la importancia y utilidad de la labor del ararteko finaliza

parlamentario para la defensa de los derechos de las personas en euskadi puede irse

la institución del ararteko es más conocida más apreciada y más demandada que cuando usted llegó es difícil

y usted la ha personalizado las quejas de los ciudadanos en dos mil trece fueron más que en dos mil doce un indicador sin duda agridulce se trata de que todo aquel que lo requiera recurra al ararteko

lo ideal sería que ningún ciudadano tuviera que hacerlo pero una queja siempre es una oportunidad de mejora que se lo digan a las empresas que hacen de la gestión de las quejas de sus clientes incluso una ventaja competitiva a través del marketing de relaciones bien gestionadas

y sus quejas en la mayoría de los casos son vitales ya que como nos muestran las estadísticas

afectan a la inclusión social pero también en menor porcentaje a la vivienda la educación y la salud el porcentaje de quejas relativas a la inclusión social

en los casos que afectan al gobierno vasco más de siete de cada diez expedientes tramitados contra el gobierno vasco afectan al departamento de empleo y políticas sociales

y sus actuaciones en materia de gestión de la renta de garantía de ingresos así como de la prestación complementaria de vivienda acaparan el protagonismo

que hoy se analiza y comenta no es un barómetro sociológico pero sí un catalizador social debe hacernos reaccionar y reflexionar a los políticos

su informe no puede dejar indiferente a ninguno de los parlamentarios que estamos aquí presentes usted mismo a ello apelando a la novedad de la situación para actualizar las políticas sociales con equidad dignidad y solidaridad el grupo popular recoge el guante

de describir la actividad del ararteko detecta necesidades que las administraciones deben atender si los parlamentarios que estamos en esta cámara

personas que quieren trabajar y no pueden personas muy preocupadas o angustiadas por su futuro el de sus hijos o el de sus nietos personas

el paro personas con la necesidad de recurrir a la solidaridad de todos si no fuera así no estaríamos en la realidad realidad

pone de manifiesto las graves consecuencias de la crisis sobre todo para los más vulnerables como lo refleja su estudio sobre la infancia

a través de nuestros valores actitudes y vida cotidiana en una sociedad con los problemas necesidades y amenazas que su informe desvela en una amplísima gama de situaciones cotidianas los políticos no una preocupación para los ciudadanos bastante tienen con las suyas compruebo con satisfacción como a su institución le mueve la transmisión de valores cívicos y la mejora de la calidad de la democracia a través de los principales y primeros agentes de socialización en informes jornadas congresos ponencias a lo largo de dos mil trece abordan estos temas desde el ararteko

políticos nos atañe la clave está en la ejemplaridad pública tan magistralmente analizada por el bilbaíno javier gomá premio nacional de ensayo esta es la senda para reivindicar

hace énfasis en su informe la sociedad decente que pone en valor la ética individual y colectiva y el interés o bien común

lo prolífico de su informe anual la limitación de tiempo y el resto de intervenciones me impiden detenerme y explayarme en aspectos que al grupo popular le merecen toda la consideración me refiero al capítulo dos de su informe relativo a las actuaciones del ararteko en defensa de los colectivos

enfermos reclusos inmigrantes homosexuales víctimas del terrorismo sí quisiéramos sin embargo

el compromiso como grupo popular al que su informe invita en cuanto a las personas mayores solo por el agradecimiento a su labor constante y callada

se han erigido como dice su informe en ejemplo de civismo gestión justicia equitativa coraje y responsabilidad comunitarias solo por ello estamos obligados los políticos junto con expertos a elaborar planes

y lo que conlleva en gasto social fiscalidad y necesidad de más población activa las personas mayores para el grupo popular serán una de las indicaciones

especialmente a trabajar por último y renunciando a hablar de muchas cosas mi grupo quiere destacar la labor divulgativa y científica de su institución a través de informes cursos estudios y jornadas dice mucho de usted

también es de reseñar su constante labor de retroalimentación con la sociedad a través de las relaciones con organizaciones sociales e institucionales sus informes y apelaciones se han convertido en referentes para el buen gobierno y para todas las administraciones a ninguna administración

de un informe anual del ararteko y eso se debe a la autoridad de la institución que usted dirige todos ganamos con ello ciudadanos ararteko y responsables

se ha actualizado se ha innovado ha aumentado su autoridad

a la tan demandada y deseable transparencia aunque la misma apunte

la sociedad de la transparencia a una falta de confianza ciudadana

los políticos y las administraciones tenemos que revertir con nuestras actuaciones diarias esa correlación

y no una necesidad desesperada por recuperar la confianza de los ciudadanos por último quisiera terminar mi intervención citando

ente el pleno del ayuntamiento de bilbao el cambio es ley de vida

se perderá el futuro su informe anual ararteko

pero constata cambios y apunta tendencias y necesidades para el futuro al grupo popular su informe no nos deja indiferentes nuestras propuestas de políticas públicas tendrán muy en cuenta las invitaciones las recomendaciones y las advertencias que su institución nos brinda

su trabajo y el de su equipo las personas pasan y las instituciones quedan la institución del ararteko queda

más fortalecida y los vascos se lo agradecemos muchas gracias eskerrik asko

egun on guztioi ayer mismo se cumplieron cinco años desde que esta cámara ratificó como ararteko de la comunidad autónoma de euskadi a la persona que había sido elegida para el cargo cinco años antes en junio de dos mil cuatro

pienso que independientemente del proceso o de renovación que se abre los cinco diez años transcurridos son una buena oportunidad para hacer balance en mi intervención voy a analizar algunos aspectos no se pueden tocar todos pero

y que muestran de una manera más clara la evolución

partiendo de la base de que la labor del ararteko tiene como una de las misiones fundamentales la de responder a las quejas que los ciudadanos y las ciudadanas interponen ante los diferentes niveles de la administración

en estos momentos de penuria resulta más necesaria que nunca la labor que desarrolla en análisis cuantitativo de la evolución de las quejas nos da unas cifras muy significativas mil quinientos treinta y uno en dos mil cuatro mil novecientos diecisiete en dos mil nueve

pero lo realmente sorprendente es que en el último periodo dos mil nueve dos mil trece se han multiplicado por cuatro tal y como se refleja

fundamentalmente a cuestiones de carácter social la gente reclama derecho sociales sus quejas

vivienda sanidad etcétera y un apartado muy importante relacionado con lanbide y su gestión de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda esto quiere decir

los efectos de la crisis y soportando las nefastas políticas económicas impuestas para salir de ella ya sé que lo que voy a decir todo el mundo lo sabe pero lo cierto es que hoy en nuestra sociedad hay más pobres que hace cinco o diez años considero que es una buena oportunidad sobre el informe anual del ararteko para denunciarlo ciertamente no es un buen balance para una sociedad que se considera integrada en el primer mundo apoyamos la labor

del ararteko para resolver estas quejas ydar satisfacción cuando es oportuno a las personas demandantes un dato significativo que puede ilustrarnos sobre la social de quien reclama amparo el ararteko

un veintisiete por ciento de las quejas en dos mil nueve subieron casi al cuarenta por ciento y sin embargo en dos mil trece solamente el diez coma sesenta y cinco por ciento se ha realizado por este medio también desde el punto de vista cuantitativo

resaltar la valoración altamente positiva superando en todos los casos el ochenta por ciento de aceptación que quienes se acercan al ararteko para reclamar o informarse hacen de la información recibida la atención dispensada la disposición para recomendar que otros se dirijan

quisiera felicitar a todas las personas que integran la institución la consecución de estas valoraciones porque sabemos que el incremente de trabajo en los últimos meses o en los últimos años ha sido impresionante

otra de las misiones fundamentales del ararteko es velar por la buena salud de los derechos de las personas en definitiva colaborar

denunciar las vulneraciones de derechos humanos y plantear recomendaciones

es una función básica del ararteko en este apartado podemos decir que si bien los problemas perduran xenofobia homofobia exclusión violencia en diferentes ámbitos etcétera

por poner un ejemplo hace diez años en euskadi el terrorismo de eta era una de las causas más flagrantes de vulneración de derechos fundamentales

como consecuencia de lo que venimos diciendo en esta intervención son otros derechos subjetivos los que se están vulnerando con más intensidad quiero poner un ejemplo porque no habría tiempo para hacerlo con todas las cuestiones referidas a esto quiero poner un ejemplo

a ciertos colectivos concretamente a los inmigrantes de malas prácticas y fraudes en definitiva estamos hablando de brotes de xenofobia

siempre que ha habido problemas sociales políticos económicos han aparecido quienes han buscado el chivo expiatorio

que pertenecen al sector más vulnerable de las respectivas sociedades no inscribir a inmigrantes en el padrón municipal o acusar a ciertos colectivos de fraude

y que se haga desde responsables públicos el fraude en la percepción de ayudas es posible que exista

como se debería hacer con todo tipo de fraude pero lo que no se puede decir es que son ciertos colectivos los que defraudan la condición de defraudador

con la nacionalidad de origen del defraudador apelamos al ararteko a que siga contribuyendo a denunciar y atajar estas prácticas la buena salud de la democracia

en esta labor en la lucha contra la desigualdad estamos empeñados los y las socialistas para acabar reiterarle el agradecimiento del grupo socialista de esta cámara

a todas las personas de la institución eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna

es evidente que esto no tenía que haber ocurrido zuk arlo honi berariazko arreta eman diozu

percibo quiebras en el contrato social hay que actualizar las políticas sociales porque la situación es nueva ados diozunarekin baina gu bezala zuk

los malos tratos infligidos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley

es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en españa lo hemos podido comprobar en estos últimos meses eta horrela da hain zuzen

eta bai iaz giza eskubideetako batzordean azaldu dugunez no compartimos la decisión de la institución del ararteko de utilizar en respuesta a los y las ciudadanas únicamente la lengua cooficial en la que aquellos se han dirigido a la administración creemos que dado su carácter público debiera impulsar el uso del euskera y realizar todas sus comunicaciones escritas

en euskadi la respuesta que se nos ha dado a esta cuestión es primar la cercanía utilizando únicamente una de las dos lenguas

no nos parece suficiente esta respuesta porque la persona en cuestión puede leer la comunicación en la lengua que se sienta más cómoda creemos que es una cuestión a mejorar

pedimos que lo mismo que cuando la comunicación del ararteko a una administración pública es siempre bilingüe la comunicación hecha a los y las ciudadanas sea siempre

al contrario de otros representantes que como no estuvieron en la comisión han tenido que comentar hoy por primera vez lo que piensan sobre el informe lo cual es una pena porque no hay posibilidad de réplica